ildo nagusiak aurkeztuko ditut voy a comenzar realizando una mención específica al programa legislativo al que me referiré más adelante en la presentación del programa de gobierno de forma más extensa en mis intervenciones

para la elaboración y aprobación del programa legislativo para la presente legislatura dos mil doce dos mil dieciséis

establece que todos los departamentos del gobierno se encuentran en este momento en el proceso de reflexión y elaboración de la documentación necesaria de cara a la presentación de sus respectivos proyectos legislativos cada departamento debe cumplimentar un cuestionario

de cada proyecto de ley que propone para la presente legislatura este cuestionario debe incluir una memoria que define el objeto de la regulación propuesta

debe incluir también una estimación de su incidencia financiera así como la previsión para su presentación al consejo de gobierno y su posterior remisión a esta cámara

y los departamentos recibieron en aquel momento un plazo hasta el día quince de junio próximo para cumplimentar esta documentación a partir de esta fecha

elaborará su propuesta de programa legislativo que será remitido a continuación

en cualquier caso tal y como he indicado el programa de gobierno que hoy presentamos incluye entre sus iniciativas un total de propiamente del gobierno

por los grupos parlamentarios y que hacemos nuestros también como gobierno recogidos también en el documento del programa de gobierno por lo que cuentan ustedes ya con una avance de los compromisos del gobierno en esta materia gobernu programa

este programa del gobierno recoge nuestro compromiso con la sociedad para la presente legislatura y es un compromiso concreto y transparente

en la definición de los objetivos y de las iniciativas es un documento público sencillo en el que hemos querido definir con claridad

las seiscientos quince iniciativas del gobierno vasco para la presente legislatura desde el punto de vista de la gestión interna hemos identificado también los responsables de llevar a efecto todas las propuestas presentadas y planteadas zein da beraz programaren abiapuntua

afrontamos el reto de superar la situación económica desde la base de un nítido planteamiento de principios y valores desde la base de la reivindicación del papel de la política y de su ejercicio

y riguroso éticamente ejemplar este es nuestro compromiso un gobierno verdaderamente comprometido con las personas beraz

el primer eje por lo tanto el crecimiento sostenible tiene su desarrollo en los siguientes apartados

una apuesta por el emprendimiento y la economía productiva la innovación clave de nuestro futuro impulsar la internacionalización el apoyo a autónomos al pequeño comercio y a la economía social

una estrategia energética a favor de las energías renovables una política territorial equilibrada y sostenible una política medio ambiental responsable las infraestructuras y el transporte sostenible una administración eficaz y transparente

y la hacienda como gestión responsable de los servicios públicos beraz lehenengo zutabe honetan ardatz honetan enplegua

nuestro primer compromiso está por lo tanto señorías con el empleo y las personas el empleo es nuestra prioridad

comenzado por la garantía en el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector público y esta es la mejor garantía de prestación de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía nos hemos comprometido también con la reactivación económica con la ayuda a nuestro tejido productivo a nuestras empresas he citado hasta ahora las cuatro primero de nuestro plan de reactivación la inversión

en este primer ámbito del crecimiento y desarrollo económico voy a hacer mención a dos epígrafes más una política medioambiental responsable

políticas que propicien un desarrollo de país sostenible y equilibrado potenciando la geodiversidad mejorando la calidad ambiental y nuestras conexiones europeas

el segundo epígrafe añadido es un gobierno riguroso en la gestión de los servicios públicos un gobierno comprometido con las normas del buen gobierno en el que la transparencia la participación y la rendición de cuentas sean parte de la señas de identidad de la gestión pública

el desarrollo humano donde nuestras políticas van a priorizar lo siguiente tal y como refleja el programa de gobierno un sistema sanitario público de prestigio y calidad

un compromiso con el euskera y la convivencia lingüística una cultura abierta y plural la juventud entendida como apuesta no solamente

el apoyo a las personas mas desfavorecidas la ayuda a las personas sin vivienda la atención a las personas mayores las familias la inmigración

y obviamente una justicia moderna el desarrollo humano las personas por lo tanto son nuestro eje de actuación

a la acción de nuestro gobierno las políticas sociales como herramienta fundamental de cohesión social entendidas así también por este gobierno

la sanidad y el sistema de pensiones el programa de gobierno incluye el objetivo de mantener un sistema sanitario público

que preserve sus valores esenciales la universalidad la solidaridad y la equidad

de nuestro sistema educativo y universitario adaptando nuestro modelo de formación profesional a las necesidades de los sectores productivos y la empleabilidad de las personas con una política lingüística que fomente el euskera de forma decidida con una política cultural propia en un entorno global

en el marco de una legislatura nos planteamos como objetivo en el desarrollo de esta legislatura impulsar las políticas que propicien

adquirimos también el compromiso de desarrollar la ley de servicios sociales

consideramos importante reconocer la contribución de la sociedad del tercer sector y planteamos por fin establecer la cartera de servicios sociales incluyendo el compromiso de su cumplimiento de su financiación por parte de las distintas administraciones públicas todo esto insisto en la perspectiva

en virtud de las circunstancias que comprometen también al propio gobierno y al departamento de seguridad en esta legislatura en las nuevas circunstancias y oportunidades que estamos viviendo adoptando las iniciativas necesarias para dotarle de una mayor cercanía y proximidad a las personas adaptándonos a la actual realidad de la sociedad vasca segundo compromiso la paz y la convivencia

vivimos una oportunidad única para la consecución de la paz en euskadi una oportunidad que debemos ser capaces de aprovechar

la base de nuestro proyecto es el reconocimiento de la dignidad humana

por tres ideas fundamentales la clarificación en relación al pasado

por principio seguiremos desde luego reivindicando desde los distintos departamentos las transferencias pendientes

ahora bien por encima de todo queremos proponer un nuevo sistema de autogobierno para dar respuesta a los retos

recogemos en este programa de gobierno de toda una legislatura las oportunidades que nos abre este nuevo tiempo

esta legislatura fortalecer nuestras relaciones con iparralde y con nafarroa recuperando el espíritu institucional de colaboración del año mil novecientos noventa y seis

nuestro programa incluye la iniciativa de constituir a propuesta del gobierno una ponencia parlamentaria sobre el futuro del autogobierno vasco

se desarrollarán unas jornadas internacionales y un proceso participativo para poner en común propuestas e iniciativas vinculadas al nuevo estatus político para euskadi

que es deseo del gobierno vasco tendrá como objetivo elaborar un texto articulado que será remitido para su aprobación a la cámara si así se acuerda en dicho grupo de trabajo y cuyo resultado en su caso será sometido a referéndum popular

recogida en nuestro programa de gobierno en el tercer compromiso de un nuevo estatus político para euskadi a trabajar en el desarrollo de la presente legislatura

principios y valores que guían el programa de gobierno que de manera resumida en sus ideas principales ideas maestras estoy presentando me van a permitir concluir por lo tanto esta primera presentación dedicando un comentario final

en la idea del compromiso con las personas la primera idea

es nuestra razón de ser es el principio y es la orientación de nuestra actuación lo hemos demostrado en la elaboración del proyecto presupuestario que presentamos a la cámara destinando el setenta y tres coma nueve por ciento de nuestros recursos disponibles

y al de los servicios esenciales de sanidad educación y protección social vamos a mantener estos parámetros y esta prioridad en que el centro de la acción de este gobierno

y muy especialmente en estos momentos de inicio de andadura en esta legislatura autonómica nos debemos a las personas nos dirigimos a las personas somos personas como servidores públicos somos personas que escuchan

personas que hemos asumido un compromiso con la sociedad para estos cuatro años y que nos debemos a esta sociedad esta es la base el fundamento y la orientación de nuestro gobierno somos como decía antes representantes de un partido político que sustenta este gobierno el partido nacionalista vasco un partido humanista por lo tanto somos

este compromiso con las personas encuentra en el más inmediato futuro del objetivo central de garantizar la reactivación económica y la generación de nuevas oportunidades de empleo esta es la mejor inversión en la cohesión social de nuestra comunidad de cara al futuro y en este empeño el gobierno vasco está trabajando y está en el espíritu y la letra de la propuesta de acuerdo

el gobierno por lo tanto ha comprometido no solamente en lo que es su programa de gobierno sino en

y lo va a poner en marcha o va a intentar ponerlo en marcha un plan de reactivación económica de manera conjunta con agentes

agentes económicos y agentes sociales la clave es centrar el esfuerzo de la acción del gobierno en aunar recursos para recuperar el crecimiento y el desarrollo esta es mas allá de lo que o más acá de lo que es un programa de gobierno de legislatura una tarea central para estos próximos meses un plan

una ayuda a la internacionalización de las empresas el impulso a la innovación y extender al máximo las posibilidades de inversión pública

a partir del próximo año estas son las medidas

y cuanto antes acordemos la inversión en reactivación antes la haremos efectiva y antes volveremos a la creación de empleo objetivo central del gobierno para sus dos

el gobierno está comprometido con este plan de reactivación económica que sintetiza el espíritu de un programa centrado en responder a las demandas y necesidades de la sociedad vasca por lo tanto reitero nuestro ofrecimiento abierto político e institucional para acordar y reforzar estas medidas entre todos bien

del programa de gobierno con vocación de legislatura completa y este es por lo tanto el programa de gobierno para la sociedad que presento aquí ante ustedes en esta cámara abierto por lo tanto a todas las aportaciones constructivas

de sus objetivos es por ello por lo que estaré encantado de recibir todas las propuestas que se quieran adecuar a lo que es este programa presentado por el gobierno vasco entendiendo que en esta legislatura tenemos que dar todos lo mejor de nosotros mismos hau da laburbilduta

señoras y señores consejeros me va a permitir señor lehendakari que comience haciendo un balance de estos cinco meses de gobierno y del camino que usted ha transitado durante estos cinco meses tengo que decirle señor lehendakari que estos cinco meses

por una prepotencia absoluta ustedes están en una soledad absoluta y es evidente que a día de hoy

más que fracasos estos cinco meses se han caracterizado por la política y por la inacción en materia económica este gobierno se ha caracterizado por la parálisis este gobierno se ha caracterizado

partidos políticos estos cinco meses se han caracterizado por recortes que ustedes han pretendido impulsar a través de este proyecto de presupuestos que finalmente no ha llegado a aprobarse y estos cinco meses

por la negativa suya y de su gobierno de impulsar todas las medidas que euskadi necesita para modernizarse y salir cuanto antes

este es el balance que nosotros hacemos sobre estos cinco meses de gobierno fracaso absoluto soledad absoluta e inmensa prepotencia

falta de diálogo y falta de negociación con el resto de partidos políticos efectivamente ahora nos presenta su programa de gobierno una especie de reseteo de la legislatura vuelta a empezar usted cinco meses después se presenta en este parlamento sin apoyos

sin bagaje que ofrecer sin logros obtenidos y recién retirado su proyecto de presupuestos mientras tanto el desempleo sigue creciendo en euskadi

se acelera cada vez estamos peor y su gobierno señor lehendakari está paralizado está solo y está sin apoyos

certidumbres y no vacío institucional y usted señor lehendakari usted y su gobierno durante estos cinco meses no han hecho nada

usted fue elegido lehendakari el pasado día trece de diciembre de dos mil doce hoy es día dos de mayo de dos mil trece la pregunta que le hacemos es cuándo va a aterrizar usted señor lehendakari han pasado casi cinco meses desde que usted fue elegido lehendakari

de setenta y cinco continúan en minoría ya es hora de que se vayan dando cuenta de que son un partido como los demás de que se encuentran en franca minoría

y qué va a hacer este gobierno y con quién se supone que lo hará puede usted decirnos de una vez qué es lo que pretende qué objetivos tiene cuáles son sus compañeros de viaje para hacer exactamente qué qué objetivos tiene y cuáles son sus compañeros de viaje para intentar alcanzarlos qué apoyos tiene usted para sacar adelante este programa de gobierno que usted nos ha presentado cinco meses y euskadi sigue sin saber qué pretende hacer qué va a hacer este gobierno y con quién se supone que lo hará

cinco meses en absoluta soledad cinco meses sin alcanzar un solo acuerdo ni en fiscalidad ni en materia presupuestaria

euskadi señor lehendakari no puede esperar el desempleo sigue creciendo la situación de los ciudadanos es cada día que pasa peor la crisis económica se agrava las grandes reformas que necesita euskadi siguen paralizadas

no tenemos ni reforma fiscal ni tenemos en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal ni tenemos en marcha la reforma del entramado institucional ni la racionalización ni el redimensionamiento del sector público empresarial ni impulso de la actividad económica

cinco meses absolutamente inactivos usted presentó un proyecto de presupuestos que toda la oposición por unas razones u otras criticó

un supuesto proceso de diálogo y negociación que no fue más que puro teatro no hubo ni diálogo ni hubo

fue una especie de teatro o de tomadura de pelo incluso el propio presidente del partido nacionalista vasco viene a decirnos recientemente en ningún momento este gobierno tuvo ningún tipo de intención de pactar los presupuestos con upyd esto nos parece una falta de respeto inmensa por qué nos hicieron perder el tiempo por qué nos convocaron a esas reuniones por qué nos dijeron que era posible el acuerdo por qué

de respeto nosotros propusimos nuestras propuestas

nosotros dimos argumentos para mejorar ese proyecto de presupuestos y a los dos días de que usted retire ese proyecto de presupuestos porque no tiene ni un solo apoyo

que en ningún momento el gobierno pretendió porque no quería pactar nada con upyd una falta de respeto evidente a la oposición política ustedes nos presentan un programa de gobierno basado efectivamente en tres puntos empleo y personas

y un nuevo estatus político para euskadi respecto al primer punto es un compendio de lugares comunes sin concreciones

y humo sin nada de fuste sabemos lo que ustedes pretendieron hacer porque conocemos el proyecto de presupuestos

de tratar de sacar a euskadi de la crisis económica sin recortes sociales sino más bien todo lo contrario

la posible salida de la crisis y por lo tanto entra en clarísima contradicción con lo que ustedes nos dicen ahora que se pretende hacer dice que ustedes piensan

iba justo en la línea contraria no servía para impulsar la actividad económica no servía para crear empleo

le pedimos a su gobierno que lidere la derrota definitiva e incondicional de eta esto es lo que tiene que hacer este gobierno liderar la derrota definitiva e incondicional de eta sin ningún tipo de cambalache antidemocrático

con justicia y con memoria y sin ningún tipo de impunidad

de la pretensión de impulsar un nuevo status político para euskadi con quién va a hacer esto señor lehendakari con quién va a intentar avanzar hacia la independencia con quién va a intentar sacarnos de españa y sacarnos de europa con quién va a pactar consulta popular ilegal que nosotros lógicamente rechazamos qué apoyos tiene para llevar a cabo

que en absoluto puede ser considerado prioritario esta es por lo tanto la pregunta señor lehendakari todo esto que usted pretende hacer

con quién va a hacer todo esto y quién quiere hacer todo esto con usted esta es la otra pregunta quién quiere hacer todo esto que usted propone con usted

qué vale su programa de gobierno o el pacto de estabilidad

ofrece a una parte de este parlamento qué parte de este programa formaría parte del pacto de estabilidad que ahora ofrece a algunos partidos políticos de esta cámara y todo este tiempo perdido señor lehendakari

sin diálogo y sin negociación sin propuestas serias sin medidas que saquen a euskadi de la crisis señor lehendakari esta especie de reseteo de la legislatura esta especie de intentar empezar de cero y para hacer qué insisto

y con quién y qué apoyos tiene usted cuáles son los apoyos que tiene pero el asunto es que no sabemos qué vale y qué futuro tiene este programa de gobierno porque efectivamente e insisto no tiene con quién llevarlo a la práctica y porque quienes pudieran acompañarle no lo aceptan no aceptan este programa en fin lo cierto es que ni siquiera sabemos qué va a hacer este gobierno mañana ni con quién va a hacer algo a partir de mañana queda todo

minoría y no sé si ustedes se han dado cuenta del asunto o no pero cinco meses después no han conseguido ningún tipo de acuerdo y siguen en absoluta minoría usted ha ofrecido recientemente un pacto de estabilidad cinco meses después de iniciada la legislatura usted ha ofrecido un pacto de estabilidad señor lehendakari para hacer qué con qué objetivos

para impulsar qué cambios para defender una reforma fiscal o para dejar la fiscalidad como está para defender los servicios públicos

para reformar la arquitectura institucional de euskadi o para sostener el foralismo y el entramado institucional que padecemos para cerrar los chiringuitos o para repartírselos para impulsar la actividad económica o para laminarlo todo para defender más autogobierno

defender más igualdad en el conjunto de españa y europa nosotros rechazamos obviamente cualquier tipo de pacto de estabilidad que sirva

hacia la independencia y sacar a euskadi de españa y de europa no puede usted contar con upyd para impulsar recortes sociales

contar con upyd para dejar las cosas como están no cuente con upyd para mantener el modelo foral no cuente con upyd para avanzar en el autogobierno no cuente con upyd para ninguna consulta popular que pretenda avanzar

y romper la convivencia nosotros lógicamente no estamos para acompañar

las ideas del nacionalismo sino precisamente para evitar que se lleven a cabo y para cambiar las cosas y para impulsar aquellas políticas y aquellas medidas

de la crisis nosotros tenemos claro cuáles son los retos de euskadi impulsar una reforma fiscal que sirva para garantizar el estado del bienestar

poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal reformar profundamente el entramado institucional puesto que el sistema foralista no funciona y ha fracasado racionalizar y redimensionar el sector público empresarial impulsar medidas para luchar contra la crisis

incentivar la actividad económica apoyar el tejido productivo y relanzar la economía e impulsar medidas que aumenten la calidad de nuestra democracia y una ley también de transparencia obviamente lograr la derrota definitiva de eta sin cambalaches antidemocráticos sin impunidad

las ideas totalitarias modernizar euskadi evitando aventuras soberanistas que nos saquen de españa y europa upyd tiene claro qué es lo que upyd quiere el problema es que ustedes o no saben lo que quieren o no pueden llevarlo a cabo y están solos y no tienen compañeros de viaje este es el asunto y el gran drama a día de hoy cinco meses después nos presenta un programa de gobierno que ni siquiera puede llevarlo a la práctica señor

usted se ha mostrado absolutamente incapaz de gobernar durante estos cinco meses usted se ha mostrado claramente incapaz de liderar euskadi

usted se ha mostrado absolutamente incapaz de tejer ningún tipo de diálogo o acuerdo con el resto de formaciones políticas usted sigue en la más absoluta soledad y se ha mostrado incapaz también de aprobar sus primeros presupuestos por lo tanto cinco meses después usted señor lehendakari sigue en clara minoría y sin apoyos y ya sabe lo que se le pide

apoyos si no es capaz de liderar euskadi creo que usted señor lehendakari debería decirlo cuanto antes gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta muy buenos días señor lehendakari señorías

cinco meses de gobierno que se resumen en cinco meses sin iniciativa política cinco meses de improvisación constante que han dejado en evidencia la debilidad y la incapacidad política de su gabinete

y cinco meses esperando a que usted asuma la responsabilidad y la iniciativa que le corresponde de su intervención esta mañana se desprende

y mucho empeño por ignorar un comportamiento político rácano y falto de compromiso un nuevo intento por echar balones fuera y trasladar a esta cámara y a la ciudadanía vasca que su gobierno tiene controlada la gestión del país cuando hay numerosas evidencias que indican lo contrario

es una idea cada vez más instalada entre los vascos más instalada entre la mayoría de la sociedad vasca

la huella de su gobierno que ha dejado desde la toma de posesión allá por el mes de diciembre de dos mil doce una actitud política dubitativa

que está condicionando su acción de gobierno y su propia capacidad de gestión asuma que esa es una realidad en la que se ha movido su gobierno en este tiempo superado de manera permanente por los acontecimientos y sin dar muestra alguna de reacción o de respuesta en ningún momento usted como lehendakari

para liderar el país y para ocuparse de las cosas que son importantes su credibilidad hoy está en cuestión usted ha estado durante todo este tiempo más pendiente de no equivocarse que de gestionar más atento a sortear la crítica política

más preocupado de guardar la imagen de su gobierno que de afrontar los problemas de los ciudadanos

es que ni usted ni su gobierno han sido capaces de despegar ni demostrar capacidad institucional para gestionar el país por tanto

no pasa nada porque sí pasa ataje el problema de raíz y asuma que necesita un suelo estable para poder gestionar con garantías

y que además necesita afrontar la responsabilidad de gobernar con una actitud muy distinta a la demostrada en estos primeros cinco meses por el bien de este país es el momento de que haga una reflexión honesta señor urkullu

dé un paso adelante y empiece a buscar los apoyos para consolidar un suelo político estable

las iniciativas que necesita euskadi para sacar adelante los retos a los que nos enfrentamos los vascos y poder afrontar en mejores condiciones una situación difícil y comprometida es preciso que también haga un ejercicio de humildad

y de responsabilidad política y no siga en el callejón político en el que está hoy recupere el pulso que en otras circunstancias usted ha exigido no insita en ver el país desde la barrera como si la responsabilidad fuera de otros y no suya

como si no pasara nada porque sí pasa a usted le corresponde tomar decisionesy hacer un análisis riguroso de lo que necesita este país

no proteja tanto la imagen dé un paso adelante y asuma el desgaste político porque supone gobernar en circunstancias como las actuales el asumir un desgaste político porque esa es su obligación

que es tomar decisiones mire señor lehendakari la situación en euskadi no puede permitirse ni un lehendakari ni un gobierno

a posar y a contar las cosas que quieren hacer este país necesita resultados y a usted le corresponde liderar la búsqueda de los apoyos políticos avanzar en la gestión política y económica del país salga de ese voluntarismo hueco en el que se refugia y pase a los hechos y a la acción política ponga de una vez los pies en el suelo y asuma que su obligación es buscar soluciones para garantizar la estabilidad que se necesita para gobernar y para eso necesita alcanzar acuerdos nada de esto va a llegar

poniendo tierra por medio usted es el lehendakari y el que tiene la obligación de marcar el rumbo y ser consciente también de que necesita

decisión para gobernar y sacar las iniciativas que este país necesita no busque en actitudes de los demás la justificación para no hacer lo que le corresponde

sin victimismos si euskadi hoy no tiene presupuesto es en buena parte debido a la incapacidad de su gobierno para buscar el respaldo político necesario

intentar porque a ustedes les ha faltado actitud desde el minuto uno del trámite presupuestario han acudido sin convicción alguna de entendimiento dando a entender que les daba lo mismo una cosa que otra se han sentado a negociar sin ningún entusiasmo ni disposición para sacar adelante

como si las cosas tuvieran que llegar solas y así es imposible convencer y ganarse ningún respaldo por eso han recogido

el presupuesto lo pinten como lo pinten ustedes no han sido capaces de sacar adelante el interés presupuestario de este país porque desde el principio

asuma esa responsabilidad señor lehendakari la suya propia no ignore la realidad no tenga miedo a decir las cosas como son y ponga todo su esfuerzo en darle la vuelta a una situación que claramente es mala para el conjunto de los vascos

evidentemente que la decisión de bloqueo político del partido socialista bildu

upyd dejaba poco espacio para el acuerdo hay que decirlo con claridad desde esa actitud de revanchismo político es difícil concluir con razones y algunos han olvidado pronto cuáles son las necesidades que tiene euskadi en estos momentos muchas de ellas las mismas por cierto

pero han preferido cobrarse las facturas políticas pendientes que tenían con usted y lo han hecho a costa de sacrificar unas cuentas que mejoradas con las aportaciones oportunas

algunos han visto en la tramitación presupuestaria una oportunidad de desquitarse de sus más de tres años de oposición política pero lo digo

eran intentarlo y trasladar una imagen de mayor solidez política y de mayor compromiso que la que han dejado entre los ciudadanos y la opinión pública de este país usted ha salido derrotado a negociar unos presupuestos y desde esa posición

adelante cinco meses después de dibujar en este parlamento

un escenario de emergencia nacional el resultado de su aportación política en fracaso un fracaso político que evidentemente es también un fracaso económico y social porque con la retirada de los presupuestos

para afrontar una realidad hartamente complicada por eso resulta tan difícil de entender esa falta de empuje y de liderazgo en el lehendakari en su gobierno tanto como el bloque decidido por otros

ni unos ni otros han estado a la altura de lo que hoy necesita euskadi

han agrandado un escenario de inseguridad e inestabilidad política que castiga el interés de los vascos y lo que toca en estos momentos

asuma de manera inmediata la responsabilidad de acordar para generar la seguridad en la que necesita apoyarse para desarrollar una gestión de gobierno

confianza y seguridad en los sectores que pueden tirar del progreso en euskadi

euskadi necesita consolidar un suelo político firme basado en el compromiso

su actitud y que su actitud sea otra bien distinta a la de estos cinco meses anteriores saquemos el interés de euskadi de la lucha política entre partidos demuestre que cree en ese plan de estabilidad política que el propio antonio basagoiti le planteaba a usted y al partido socialista este fin de semana pasado y que públicamente usted se ha comprometido a llevar adelante sin hipotecas partidistas desde la responsabilidad política que nos corresponde y con auténtica vocación de país porque es bueno para euskadi porque es necesario para los vascos

póngase a la cabeza para buscar los acuerdos y demuestre que cree en ese pacto de estabilidad un pacto de estabilidad política que se asiente en la corresponsabilidad en el acuerdo y el compromiso político en el marco de una situación excepcional que nos debe llevar

excepcionales ese pacto es posible y además necesario lo contrario son los meses en los que venimos y eso no es bueno para los vascos

con sinceridad con autenticidad admitiendo nuestras diferencias y nuestras limitaciones pero asumiendo que estamos en un momento que nos obliga a tirar del carro a quienes tenemos un compromiso claro con la estabilidad institucional de euskadi

son asuntos de país está en juego nuestro crecimiento económico la capacidad de expansión de nuestras empresas está en juego el futuro de más de una generación de vascos que necesitan formarse

de mayor certidumbre no estamos en un momento cualquiera un pacto de estabilidad sin contraprestaciones y sin precios políticos de ninguna clase sabiendo que vamos a tener que dejar pelos en la gatera no le vemos en esa actitud después de escucharle esta mañana

político para euskadi un compromiso de país claro

porque es un instrumento útil y al servicio de la sociedad quienes podemos garantizar la estabilidad

para poder gestionar con garantías tenemos la obligación de dar un paso al frente desde luego el partido popular

nosotros no nos vamos a esconder y vamos a poner todo nuestro empeño para sacar adelante algo en lo que creemos y que es necesario en estos momentos

asumir el protagonismo de su cargo en un tiempo de acuerdos y entendimientos políticos

los políticos no podemos seguir siendo un problema para lo que necesita este país los políticos tenemos que representar soluciones y ponerlas sobre la mesa

asuma la necesidad y la obligación que tiene de garantizar la estabilidad política e institucional de este país y en ese compromiso nos tendrá a su lado

con decisión y siendo conscientes de lo mucho que está en juego nosotros no vamos a pedir sillones eso se lo puedo asegurar vamos a exigir

lehendakari lo primero que quiero decirle lehendakari es que nos parece muy oportuno que

minusvalorando este parlamento sea en sede parlamentaria que es donde corresponde donde usted y su gobierno

de actuación en esta legislatura nos parece muy oportuno que visto como están transcurriendo los primeros meses de legislatura

nos vaya concretando cuál va a ser ese programa de gobierno programa que usted aseguró tener alardearon de ello permanentemente pero que hasta el presente ha brillado por su ausencia y eso ha visualizado un gobierno con una falta de iniciativa y de rumbo manifiesta

cuando renunciaron a debatir su proyecto de presupuestos que retiraron al carecer de respaldo necesario la manifestación más clara de su fracaso más de una vez ha dejado constancia de que su gobierno estaba

acción e ideas que por buscar los acuerdos imprescindibles para sacarlas

y es evidente que con la situación actual con los enormes problemas a los que tenemos que enfrentarnos como país gobernar en minoría como ustedes decidieron

pero absolutamente inapropiada si estamos en una situación de emergencia nacional como usted se encargó de repetir una y otra vez

más fuerte el más capaz y no el gobierno más débil que es el que tenemos en estos momentos

ha llevado es a que el gobierno en estos meses haya perdido el tiempo ha perdido el tiempo cuando los ciudadanos y las ciudadanas nos reclaman medidas inmediatas para solucionar los problemas más acuciantes

señor lehendakari creo que le ha llegado la hora de optar o seguir siendo víctima de su propia estrategia de partido o empezar a gobernar tal y como necesita este país y eso exige posiciones claras y rectificaciones usted ya ha podido comprobar

sus presupuestos que la vía de los recortes sociales y que renunciar al impulso de la economía y del empleo no tienen viabilidad alguna en esta cámara

a los socialistas y tampoco nos encontrará en posturas que inviten a la resignación a la desesperanza de la gente o a la parálisis del país

para que nos limitemos a decir a los ciudadanos y a las ciudadanas así es como están las cosas esto es lo que hay que es lo único que han hecho

hay que cambiar las cosas y vamos a cambiar las cosas nos eligen para decir esto es lo que puede haber para decirles que hay alternativas para salir

sin sacrificar los derechos sociales ni poner obstáculos al crecimiento por eso es importante que hablemos hoy aquí de su programa

más allá de considerar que solo la presión le ha empujado a rendir cuentas ante los representantes de los ciudadanos y ciudadanas vascas

con que esta comparecencia nos permite hablar de lo que

esencial y lamento decirle que lo que usted ha llamado programa de gobierno nos ha parecido un cúmulo de generalidades de falta de concreciones de falta de plazos de acciones inmediatas si es que ya sabemos

que hay que ayudar a los autónomos que hay que buscar la internacionalización mejorar la competitividad

que es el gobierno cómo en qué tiempo con qué medidas concretas con qué recursos eso es lo que define de verdad

el tiempo del catálogo de buenas intenciones ya ha pasado estiempo de transformarlas en acciones concretas y en acuerdos

una y otra vez desde el comienzo de esta legislatura lo contrario lo que ha hecho hoy aquí esas generalidades esa falta de contenido solo nos arroja un titular surrealista el gobierno en su presentación del programa certifica que no tiene programa no ha habido más

desde el inicio de la legislatura estamos proponiendo acuerdos de país empezando por uno que es radicalmente urgente un plan inmediato

de choque que frene primero la sangría de despidos

empezar a crear empleo y para eso hay que adoptar iniciativas debatirlas

con los grupos políticos con los agentes sociales con los sindicatos

hay que buscar acuerdos en este país y hay que buscar el soporte político necesario y dotarlo del apoyo económico público suficiente

fórmulas por las que cesen los ere de empresas en dificultades que se busquen salidas para que una empresa viable

hay que dar sustento a las nuevas iniciativas con perspectivas a las que generan conocimiento a las innovadoras porque serán el empleo

inmediato hay que apostar por la formación de los desempleados y activos como principal herramienta para adaptarse a las nuevas necesidades productivas todo esto y mucho más debe formar parte de un plan de choque pero con plazos con objetivos medibles

pero le recuerdo que sus presupuestos los que retiró la semana pasada precisamente en todo esto de lo que ha hablado esta mañana en políticas de empleo

en investigación en infraestructuras recortaban todas esas partidas todas más de un cincuenta por ciento

por lo tanto no se comparece en nada lo que usted ha dicho aquí esta mañana con su acción política que pretendía llevar a la práctica

que tuvo que retirar la semana pasada los socialistas creemos además que hay que blindar los servicios públicos

y las prestaciones sociales que se debe de cerrar un compromiso expreso

la sanidad la educación gratuita y universal y de calidad son la garantía de la igualdad y de la cohesión social la protección social

para impedir para evitar que nadie se quede abandonado a su suerte en este país y por lo tanto preservarlos hoy y hacer las reformas necesarias para que sean sostenibles mañana

es lo que conseguirá garantizar los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas de este país

de solidaridad y de justicia social que cuando se salga de esta crisis permitirá que se haga desde la igualdad de oportunidades y no a costa

y otros ni siquiera estén para ello usted lo ha dicho hay que mantener el empleo público ya pero yo le digo que hoy cinco mil o más de cinco mil empleados públicos ven en riesgo su trabajo

de rajoy ha puesto en marcha y que ha sido entusiastamente apoyada por su gobierno

empezar a trabajar para hacer la contraria mantener el empleo público el empleo público

y asistentes sociales son personas que trabajan atendiendo los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y que a su vez con su trabajo perciben salarios pagan impuestos

es en el que nos queremos meter los socialistas no en el que acaba con los servicios públicos y con el empleo público no en el que acaba con menos derechos y más desempleo queremos el del fomento de los derechos sociales a través del sistema público en los que trabajan los profesionales que contribuyen a que esos derechos sean posibles

en esta cámara que nos neguemos a aceptar la tesis de que el sistema no es sostenible que no queda otra mas que recortarlo no no

estamos dispuestos a hablar de qué servicios públicos qué prestaciones son intocables dónde están de verdad la línea roja en medio de la crisis y cuales por no ser imprescindibles por no ser urgentes podemos dejar en stand by hasta que lleguen tiempos mejores estamos dispuestos

futuro sino también el de nuestros hijos qué herencia dejamos además los socialistas proponemos una revisión profunda del entramado institucional

ya existe el mandato parlamentario para hacerlo y tenemos que poner en marcha sin dilación la ponencia que acordamos la pasada legislatura hicimos parte del recorrido

ya contamos con la opinión de los expertos de todos los niveles de todos los colores

conclusiones y pongámonos a trabajar en un plan que permita clarificar el panorama revisar nuestras actuaciones emprender todas las acciones

y que cada euro que dejan en nuestras manos resulta absolutamente eficiente y para ello habrá que revisar todas las leyes que haya que revisar las leyes deben estar al servicio de la ciudadanía y adaptarse a las necesidades de esta no al revés

en base a criterios políticos y en ocasiones partidarios revisémosla ahora en base a criterios sociales a criterios de eficiencia para tener un país moderno como el que reclama y necesita la sociedad vasca

como actuación inmediata y paralela los socialistas consideramos absolutamente imprescindible una reforma integral de nuestra fiscalidad es imprescindible

que acabe con trampas y trucos que permitan el fraude y la ilusión es imprescindible que la reforma sea global en vez de seguir buscando apaños cada año

es imprescindible que parta de un acuerdo amplió del acompañamiento de todas las instituciones la actual legislación permite que esta cámara sea donde se sustenten esos acuerdos que esta cámara sea la que fije los criterios

sobre los que desarrollar las correspondientes normas y este acuerdo de fiscalidad

es el que va a permitir contar con los recursos necesarios para desarrollar todas las demás políticas en favor del empleo las del blindaje de los servicios públicos

mientras que el acuerdo del entramado institucional nos va a permitir ganar en eficiencia a la hora de utilizar esos recursos los socialistas pensamos que estas tienen que ser las bases sobre las que

sustentar los acuerdos de ciudadanía que necesita euskadi y esos acuerdos están en nuestras manos forman parte de nuestras competencias este es el autogobierno y no perdernos en abstracciones vacías

no no el ejercicio del autogobierno hoy el que nos demanda hoy la ciudadanía vasca es utilizar

para hacer posible los objetivos de progreso de bienestar general para salir de la crisis y ahí debemos de volcar nuestros esfuerzos lehendakari el gobierno ha perdido cinco meses pero

de la legislatura y para ello tiene que ser consciente de la realidad y de su realidad la realidad es que en este tiempo

a esta cámara cero planes dos leyes una ley fue la del adelanto de las pagas extras de los funcionarios

y la retiró sin embargo la oposición en general y los socialistas en particular

mucho más dinámicos estamos trayendo muchas más iniciativas muchas más ideas muchas más propuestas de las que hasta ahora ha planteado el gobierno

lehendakari sobre lo que tendrían que reflexionar seriamente porque nos habla de su falta de liderazgo de la falta de iniciativa de este gobierno y esto es preocupante

parados para los cientos de desahuciados para las decenas de miles de personas que deberán hacer frente al copago farmacéutico para los estudiantes que ven limitados su acceso

para los investigadores que ven en peligro sus proyectos de investigación y de vida es hora de que el gobierno se ponga a ello que busquen que sus proyectos

las acciones necesarias sino busquen el respaldo que necesitan para sacarlos

a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país repito los socialistas estamos dispuestos a acordar a hablar con este gobierno pero no en beneficio del gobierno
sino en beneficio de la sociedad vasca eskerrik asko lópez jauna

tienen una disociación entre lo que quiere

y lo que en realidad es empecemos por el principio

el empleo y las personas las personas primero

que el empleo es lo primero y simultáneamente reducir en casi un veintiséis por ciento las partidas destinadas a la creación de empleo

no puede poner como eje de su programa a las personas y reducir setecientos once millónes de los mil ciento treinta y dos

este presupuesto es decir más de un sesenta y dos por ciento en las políticas sociales qué credibilidad puede tener un plan a favor del empleo cuando el gobierno

está destruyendo empleo cómo se puede creer que su principal objetivo sea crear puestos de trabajo cuando priva de trabajo

la condena al paro de los eventuales la falta de sustituciones en el empleo público

la amortización de jubilaciones estas son maneras

a las personas si el empleo no es capaz de mantener los puestos de trabajo de las personas que dependen de sí mismo o del propio gobierno cómo se puede creer que es capaz de crear nuevos puestos de trabajo ezin da esan pertsonak

ezin da moztu hezkuntzarako aurrekontua las personas esas personas que pretende defender este gobierno se están quedando sin trabajo diez mil más paradas y parados desde

a gobernar la jaurlaritza actual los derechos de las trabajadoras de los trabajadores menguan

hasta casi desaparecer la precariedad se está volviendo

solo un cinco por ciento de los nuevos contratos son estables

qué va a hacer en concreto ante la amenaza de la ultra actividad de los convenios colectivos

va a condenar a miles de vascas a miles de vascos a un sueldo de seiscientos cuarenta euros y una pérdida drástica de sus derechos laborales todavía se está a tiempo organice un plan de emergencia pero un plan de emergencia real sincero eficaz y sin exclusiones y ahí estaremos para trabajar codo con codo y por cierto es incomprensible

se ha autoexcluido de participar en un pacto de país porque apoya la huelga general del treinta de mayo no sé la verdad a quien se le ha podido ocurrir

los presupuestos se retiraron quince horas antes de ser presentados en esta cámara en un principio se justificó la retirada de los presupuestos porque había noticias frescas

de un nuevo límite de déficit noticias tan frescas que ya habían sido escritas en un papel dos semanas antes en el documento que el lehendakari entregó a los grupos parlamentarios en veinticuatro horas se cambia la razón de la retirada de los presupuestos y la razón pasa a ser que la oposición se había puesto de acuerdo

a los dos días desaparece otra vez la motivación inicial respecto al déficit porque el propio lehendakari anuncia que no gastara ni un euro más de los

que estaban presupuestados en un inicio a pesar

porque contemplaba modificar el apartado de ingresos a cuenta del déficit que

para este viaje no se necesitaban alforjas con la retirada de los presupuestos supuestamente el gobierno se ha quedado

que además se dijo que estaban condicionados a la aprobación

es decir hablo del plan de empleo y hablo del fondo

pues habrá que hacer algo habrá que hacer algo habrá que diseñar este plan de emergencia gure ustez lau ardatzen inguruan

akordio batera eltzea segundo punto que tenía que atajar este programa de emergencias la fiscalidad es un asunto y dar la vuelta a las medidas que desde el año dos mil ocho se han ido tomando en beneficio de las rentas más altas establecer medidas fiscales ecológicas una fiscalidad que favorezca al alquiler y por resumirlo

justa progresiva y que se intente acercar a la media de la comunidad económica europea que tiene un treinta y seis coma seis mientras que en hego euskal herria la fiscalidad es de un treinta y uno coma cinco si nos acercáramos a la presión europea a la media europea eso supondría unos ingresos más de seis

hacer una política de protección social manteniendo el gasto público sin hacer ni un solo recorte resulta sangrante

y simultáneamente ver cómo se recorta en gastos sociales es para sonrojarse

que después se haya acudido al voluntarismo de las entidades financieras y que no se

una presión directa sobre la entidad que tiene que ser la que responda de la financiación de la comunidad que es precisamente kutxabank

en el programa electoral del partido nacionalista vasco desaparecía en su programa de gobierno ha vuelto a aparecer hoy aquí en esta cámara

aspectos fundamentales que se decían entonces un proceso participativo un referéndum una consulta popular a la cual se iba a convocar para preguntar la opinión de la ciudadanía y una fecha concreta

esa es la realidad yo creo que esa es una de las claves que ayudan a interpretar lo que está sucediendo tan claro lo tenía

que incumple su obligación de presentar un proyecto de presupuestos en esta cámara

o formulado para junio no se presentan evidentemente porque el gobierno socialista se tiene que retratar

ajustes contenciones de gasto le llaman en gipuzkoa o recortes que necesariamente iba a tener que recoger ese proyecto de presupuestos

cuál ha sido el siguiente acto político relevante del partido socialista esta dinámica la de presentar una enmienda de totalidad solo al capítulo de ingresos por qué el partido socialista

en aquel momento presidiendo el consejo vasco de finanzas cuando observa los datos de las tres diputaciones

el partido socialista el gobierno vasco carlos agirre como portavoz del gobierno vasco

y dice lo hacemos por responsabilidad política para evitar el bloqueo presupuestario de las instituciones es literal e incluso ustedes lo han recogido en su enmienda a la totalidad pero después hemos visto que sí había una estrategia de bloqueo

porque hay un razonamiento de mayor ingreso para el conjunto institucional vasco

por qué se comete la incoherencia o la incongruencia de no presentar enmienda a la totalidad a los ingresos por ejemplo

porque la decisión estaba tomada la decisión es política

para intentar negociar algo se va al capítulo de ingresos diciendo va a ver

pero no presentan esa enmienda a otras instituciones con lo cual está tomada la decisión la decisión era no y después

a vestir la decisión o la argumentación aquí se ha hablado de revanchismo de fracaso soledad

pero es que el presidente de su partido jesús eguiguren lo ha dicho recientemente en una entrevista

pero claro se está hablando del pnv cuando dice eguiguren no tenemos especial interés

es fortalecer al pnv lo dice y lo mantiene el partido socialista lo aplica se puede ubicar en gipuzkoa

porque es el alimentador político a la hora de tomar las decisiones

porque eso es fortalecer al pnv luego el objetivo es debilitar al pnv

aquí nosotros el error que hemos cometido al parecer es el haber obtenido un buen resultado electoral

el que el partido socialista se había quedado muy lejos de sus expectativas que eh bildu que iba a empatar incluso nos

pues en su escala y está upyd con todos los respetos pero los dos partidos que buscaban al parecer no sé si la alternancia

no son nuestra tabla de salvación sino nuestra alternativa seguían por el criterio de que lo importante es desgastar al pnv

nosotros no vamos hacer victimismo el problema que tiene es que lo ha visto todo el mundo

que todo el mundo de este arco parlamentario ha tenido que justificar su posición ante la negativa de los presupuestos porque todo el mundo

el partido socialista el partido popular y eh bildu sobre todo ha tenido que dar más de una explicación y va a tener que seguir dando por qué porque el partido nacionalista vasco y el propio lehendakari cuando esta presidía el ebb ya entonces y con posterioridad nosotros siempre hemos

para que en lo que se refiere a estabilidad hubiera una corresponsabilidad no en el vacío no una corresponsabilidad etérea de favorecer la aprobación de los presupuestos

no entorpecer o no impedir la aprobación de los presupuestos

lo quieren para ellos para la aprobación de los presupuestos no no

en todas las instituciones de referencia no ha habido enmienda a la totalidad presentada o no retirada a tiempo

avalado o votado enmiendas de totalidad de ninguna formación política para evitar que esa institución tuviera presupuestos y eso lo hemos hecho lo hemos practicado en las instituciones vascas el pnv ha sido corresponsal con ese principio y es el único que ha actuado de esa manera

escuchar la contestación del lehendakari después de la réplica correspondiente pero sí es evidente y yo lo digo desde la posición del grupo parlamentario mayoritario pero que estamos a once de la mayoría absoluta por lo tanto también nuestra disposición ha sido desde el primer

y al acuerdo que sí va a tener que invertir

en paciencia paciencia política y paciencia democrática porque algunas posiciones hoy por hoy por lo menos

que vayan camino de mutar cambiar o acercarse a esas zonas

herri helburuak lortu ahal izatea por lo tanto señorías sin entrar en más polémicas que nos retrotraen una y otra vez a estadios que deberían ser superados ante lo que es también el emplazamiento que por parte de los

de afrontar esta situación de afrontar entre todos esta situación la propuesta que ha hecho este gobierno ha sido transparente y abierta a la participación y a la colaboración todos los partidos políticos han tenido conocimiento directo de los proyectos del gobierno y de todos sus departamentos todos por lo tanto lo que pueda ser esa crítica de la inacción

de que todas y todos los consejeros de este gobierno han presentado

maestras que pretenden en la legislatura todos los partidos políticos por lo tanto han tenido conocimiento directo de los proyectos del gobierno y de todos sus departamentos yo mismo como lehendakari también junto con el gobierno hemos invertido

lo hemos hecho con el espíritu de poder propiciar un acercamiento y un entendimiento y creo sinceramente señorías que contamos con una ventaja porque más allá de los que sean las posiciones políticas de gobierno u oposición de cada una de nosotras y de nosotros creo que compartimos

todas y todos somos muy conscientes de las urgencias del momento

este gobierno comparte ese objetivo y la prioridad por lo tanto es la de responder a las necesidades más acuciantes de las personas y en eso nos hemos implicado también en el tiempo que llevamos de gobierno hasta la fecha somos también conscientes y compartimos

y de reactivación de la economía como en alguna crítica al proyecto nonato de presupuestos que se ha hecho

sabiendo además cuáles son los esfuerzos por planes y programas que coadyuvantes con el propio proyecto de presupuestos hemos trabajado desde el gobierno vasco la generación de nuevas

que estamos proponiendo hasta la fecha tanto en lo que es el fondo de financiación del circulante para las pymes autónomos y profesionales como también en lo que es el plan de empleo como también aquí sustanciamos un pleno monográfico sobre el empleo con las propuestas de resolución aprobadas en esta misma cámara

en cuanto a lo que son los bloques de críticas que se han planteado a la intervención inicial por mi parte en la presentación del programa

intervenciones a mi modo de ver un falso dilema entre la reflexión entre la acción entre la planificación de las medidas y su ejecución con lo que se ha planteado de la concreción y también la concreciónen plazos quiero dejar clara constancia de que este gobierno planifica y que actúa también

y este gobierno ha demostrado su capacidad con hechos con realizaciones lo hemos demostrado en los primeros días de actuación y ustedes señorías por mucho que quieran negarlo lo conocen pero les invito que consulten por ejemplo a las más de seiscientos veinticinco pequeñas y medianas empresas que solo las dos primeras semanas

un fondo de financiación del circulante para pymes autónomos y profesionales y ya en las primeras semanas ha habido más de seiscientos veinticinco pequeñas y medianas empresas que

este es un acuerdo concreto en el que han participado doce entidades financieras en colaboración con el gobierno no seré yo

con las ocho instituciones o agentes económicos y sociales que han recibido el plan de choque por el empleo elaborado por el gobierno no solamente

hemos presentado y ustedes lo saben a pesar de que no lo quieran reconocer hemos presentado un plan de choque por el empleo que lo hemos hecho llegar a ocho instituciones

lo que sean sus aportaciones ha pasado ya un mes ha pasado un mes

de una institución pública territorial que en consejo de gobierno de esa institución política y territorial haya acordado sumarse

más respuestas ustedes han conocido también señorías que el gobierno ha planteado

y comprometido un plan para el redimensionamiento del sector público nosotros hemos sido quienes hemos comprometido un plan de redimensionamiento del sector público un plan que compromete la reducción en un veinticinco por ciento en esta legislatura y sobre el que ya estamos trabajando y este es un gobierno que

la elaboración de un proyecto de presupuestos con la mayor reducción de disponibilidad económica que nunca hubiera tenido un gobierno comparativamente con los gobiernos anteriores y con legislaturas anteriores el gobierno por lo tanto señorías está actuando y el gobierno va a seguir actuando

y el gobierno va a seguir demostrando su capacidad pese a la critica de la falta de capacidad porque lo hemos demostrado va a seguir demostrando su capacidad con hechos vamos a presentar el plan renove de rehabilitación vamos a presentar la agenda estratégica de la formación profesional de euskadi dos mil quince vamos a presentar el sistema vasco de emprendimiento vamos a presentar el programa lehen urrats para propiciar primeras oportunidades de empleo para los jóvenes vamos a presentar la estrategia basque country vamos a presentar el código ético y de buen gobierno

todo esto todo esto lo vamos a hacer estos dos próximos meses y así vamos a seguir

biltzarkide jaun andreok otros de los apartados que

que se ha planteado en las intervenciones de los portavoces parlamentarios es en el conjunto de su planteamiento como recortes

como puede ser lo que es la redacción de este programa de gobierno y sin embargo realizar recortes en lo que ha sido nuestra acción en primer lugar yo quiero reiterar lo que he dicho antes que vamos a cumplir lo que hemos comprometido lo hemos hecho hasta la fecha y hemos sido muy conscientes de comprometer aquello que podemos cumplir en segundo lugar quiero insistir

no es lo mismo señorías recortar que ajustar este gobierno ha admitido que ha tenido que ajustar su presupuesto lo ha admitido además sabiendo

desde la propia campaña electoral hasta inmediatamente después de la campaña electoral lo hemos tenido que hacer exactamente en mil cien millónes de euros

de ustedes como dije en el debate de investidura cualquiera de ustedes cualquiera que fuera el gobierno habría tenido que hacer exactamente lo mismo ajustarse a la realidad

ajustarse a la realidad sí lo mismo que están haciendo las familias todas las familias y todas las empresas vascas y cuando digo todas son todas todos somos conscientes de cuál es la realidad y todos tenemos la posibilidad de hablar con diversos agentes y somos también conocedores por lo tanto

la realidad hemos sido claros en nuestros planteamientos hemos sido claros en nuestras prioridades hemos admitido que para mantener un presupuesto social para mantener los servicios esenciales para la ciudadanía como se nos reclama hemos tenido que ajustar partidas menos prioritarias en estos momentos o que hayamos tenido que priorizar unas frente a las otras hemos recibido muchas propuestas para incrementar partidas

una alternativa presupuestaria está muy bien el que cada grupo parlamentario fije su posición en cuanto a lo que puedan ser las partidas presupuestarias en el proyecto de presupuestos

presupuestaria no ha habido un planteamiento alternativo a la propuesta que hemos realizado lo único que estamos conociendo es

y sin embargo se acusa de que aquí también sucede lo mismo cuando aquí

ni va a ocurrir y esta es también una decisión política de este gobierno programarekin beraz berdin programa proposamen bat aurkeztu egin dugu

ez badira guk aurkeztutakoetan oinarritutakoak badira ere sobre las propuestas sin contenido concreto sobre la crítica a las generalidades sobre ese concepto de surrealismo que se me ha planteado también por parte incluso del partido socialista de euskadi

señorías y particularmente señorías socialistas que este es el primer gobierno que presenta un programa con este nivel de concreción este es el primer gobierno que presenta

no solamente con tal nivel de concreción señor lópez hasta la fecha este parlamento no ha recibido que yo conozca

y dudo que los partidos políticos que hablan de concreción puedan presentarnos aquí una alternativa más concreta que responda a sus diversas experiencias de gobierno lo dudo al menos yo aquí en la comunidad autónoma en euskadi no lo he conocido en cualquier caso el destinatario de este programa de este compromiso público es

los valores de la cercanía y la transparencia hemos querido acercar la interioridad de la acción de un gobierno a la sociedad queremos que se conozca lo que queremos hacer

un programa de gobierno y tal y como decía el portavoz del grupo euzko abertzalea por eso queremos también que públicamente conocido públicamente también se nos valore cuando corresponda

otra de las cuestiones que se me ha planteado es el procedimiento de alguna manera en la presentación de este programa bueno yo hoy he constatado que es más merecedor por lo que decía antes también

que un gobierno que no lo presenta incluso quien no lo presentó se afana en criticar a quien sí lo hace y se lo ha dicho también de alguna manera

del grupo popular en cualquier caso yo creo en el programa insisto este no es un programa cerrado señorías de ningún grupo parlamentario no es un programa cerrado

es un programa es una base sobre la que poder realizar aportaciones se critica quizás también arranca de lo que puedan ser las líneas maestras del programa electoral del partido nacionalista vasco evidentemente no entiendo que pueda haber una crítica en ello somos un gobierno del partido nacionalista vasco un gobierno en minoría sí de veintisiete parlamentarios sustentado por un grupo parlamentario que es el del partido nacionalista vasco y con un programa de gobierno adecuado también a lo que es también la traslación de su programa electoral

la sociedad como ha dicho el portavoz de euzko abertzaleak nos otorgó su confianza más que a ningún otro grupo parlamentario con representación en esta cámara y ahora desde el gobierno comprometemos a hacer lo que prometimos si en este camino tenemos compañeros de viaje

lo que hay que hacer se nos critica por haber dado a conocer el programa públicamente antes de darlo a conocer a este parlamento no es cierto el parlamento fue el primer receptor de este programa el primer receptor de este programa se nos critica

a las aportaciones que podamos recibir beraz programa irekita dago ekarpenei irekita prest gaude hobetzeko

una última cuestión en esta mi segunda intervención en relación a lo que es el programa legislativo ante lo que ha sido el planteamiento del grupo parlamentario

portavoz señora mintegi el gobierno en su programa ha comprometido ya dieciséis compromisos legislativos

con otras dos iniciativas legislativas que también alguna se está sustanciando como otra está acordada también entre diversos grupos parlamentarios y los dieciséis compromisos legislativos que quiero destacar en esta intervención

en cuanto al eje primero de empleo y personas los proyectos de ley que estamos dispuestos a traer a esta cámara como gobierno vasco son la ley de administración pública vasca el proyecto de ley municipal la ley de concierto económico

y que recupere la comisión mixta del concierto económico una ley de metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi en el actual quinquenio

la ley del estatuto del joven agricultor y agricultora la ley del estatuto de mujeres agricultoras la modificación de la ley de suelos contaminados la ley de puertos de euskadi en cuanto al segundo eje el del desarrollo humano queremos traer a esta cámara y ese es nuestro compromiso la revisión de la ley dieciocho barra mil novecientos noventa y ocho sobre prevención asistencia e inserción en materia de drogodependencias

la ley vasca de educación la ley de regulaciones de las profesiones del ámbito del deporte la ley de víctimas de violencia contra las mujeres y la modificación del derecho civil foral vasco en el ámbito del derecho sucesorio

la que se está tramitando ya y en la que tiene responsabilidad el partido socialista de euskadi como es la ley de aprendizaje

también a gestionar o a tramitar y a desarrollar en esta legislatura y por último

relación de los proyectos de ley que estamos dispuestos a traer

de manera acordada con los grupos parlamentarios que así lo hicieron desde la legislatura pasada el proyecto de ley de instituto de la memoria y de la

señorías estamos de acuerdo en algunas cosas que yo he escuchado aquí hoy en las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios he escuchado

que este país necesita pactos de país para salir adelante estamos de acuerdo también por lo que he escuchado en que vivimos una situación muy complicada

aun cuando quizás el copyright nos pertenezca a alguno que no a los portavoces de los grupos parlamentarios que también hoy lo constatan

podemos dedicarnos señorías a seguir discutiendo de quién ha sido la culpa de la falta de acuerdo podemos dedicarnos a seguir bloqueando la iniciativa del gobierno

la falta de liderazgo pero se reconozca también por alguno de los portavoces que ha existido una actitud de bloqueo ante la iniciativa del gobierno

podemos dedicarnos a seguir apelando al pacto y a la estabilidad pero sin intentarlo

yo propongo señorías mirar hacia adelante propongo un acuerdo de estabilidad que en mi intervención final detallaré

propongo una oferta para remar todas y todos en esta misma dirección y creo sinceramente que hoy que es el día de presentación del programa de gobierno de un gobierno

solamente pero nada más y nada menos que en veintisiete parlamentarios creo que es el momento en el que todas y todos deberíamos dejar atrás

un tiempo de precampaña y de campaña electoral y de post campaña electoral creo que tenemos que dejar aquí claro y ahora quién está dispuesto a negociar un pacto de estabilidad y quién no sobre las bases que luego detallaré en mi última intervención eskerrik asko legebiltzarkide